guztioi fiscalidad verde es correcto incentivar la transición ecológica con nuevos impuestos no se puede proteger al medio ambiente

utilizar la fiscalidad verde para reorientar la economía y alcanzar los objetivos ambientales es lo que recomiendan los principales organismos internacionales

es una reordenación impositiva orientada a determinados logros ambientales la verde es una de las áreas fiscales que mayor recorrido tiene en europa ez dira nire hitzak ezta

paolo gentiloni europako ekonomia komisarioarenak

están en el centro de nuestra estrategia de recuperación en este contexto una revisión de nuestras políticas tributarias

más fuertes que antes ahí es donde la fiscalidad verde puede tener un papel baina zer dira ingurugiroko zergak zer da fiskalitate berdea de acuerdo al marco estadístico desarrollado conjuntamente por diversos organismos internacionales

de algún material que tiene un impacto negativo comprobado y específico sobre el medio ambiente gure kasuan eta gaur hona ekartzen dugun legearekin zergapetu nahi duguna da

bultzatzerakoan los beneficios de los impuestos ambientales están reconocidos ampliamente en la literatura la academia y también centros de decisión políticos la fiscalidad ambiental se define como una herramienta clave para avanzar hacia una economía descarbonizada que favorezca el desarrollo sostenible y entre

internalización de las externalidades negativas es decir aquellos agentes que en su actividad realicen una contaminen o provoquen un daño al medio ambiente deberán

y es verdad que la primera pregunta a la que tenemos que responder es si se puede establecer una ley de este tipo el orden lógico del razonamiento no sería eso primero sería pensar si queremos hacerlo si es conveniente hacerlo y luego analizar si es posible jurídicamente

creemos que es necesario pasar la primera prueba la prueba de la viabilidad jurídica de este tipo de normativa porque si no evidentemente si supiéramos que no tiene recorrido y que nos la iban a tumbar

pues bien se puede establecer un impuesto de este tipo sí sí se puede de hecho ya está establecido en varios lugares y de hecho ese impuesto ya ha pasado

de los tribunales cataluña asturias aragón y navarra tienen

desde una perspectiva medioambiental y como era previsible este tipo de imposición fiscal ha provocado un intenso un intenso recorrido judicial

judicial que nos puede afectar desde los tribunales superiores de justicia autonómicos el tribunal constitucional el tribunal supremo y finalmente el tribunal de justicia de la unión europea aquellas empresas fundamentalmente enemigas de la imposición medioambiental de los grandes centros comerciales generalmente empresas de ese ámbito han argüido que

para los establecimientos de menor tamaño que no era competencia autonómica establecer un impuesto de esta naturaleza que limitaba

afektatzen gaituztelako eta horiek bai jurisprudentzia sortzen dutelako el tribunal constitucional en dos sentencias en el año dos mil doce y el dos mil catorce

sea discriminatorio y una doctrina que quizás jocosamente podríamos denominar como el tamaño importa dice que precisamente es la agrupación de comerciantes en grandes establecimientos

externalidades negativas sobre el territorio el medio ambiente y la trama del comercio urbano por tanto no es discriminatorio poner impuestos específicos en función

en dos mil catorce en otra sentencia va mucho más allá y desmonta por completo todos los argumentos esgrimidos por las

la legalidad de estos impuestos el tribunal constitucional dos mil catorce sentencia que este tipo de impuestos no vulneran el artículo ciento cincuenta y siete punto tres de la constitución

ni el artículo treinta y uno punto uno que habla de la justicia tributaria

ha dictado varias sentencias una de las más relevantes en junio de dos mil diecinueve donde de un golpe desestima cinco recursos presentados por el corte inglés contra la normativa asturiana que regulaba este impuesto y lo hace de forma tan categórica que obliga a el corte inglés al pago de las costas y lo hace además

supremo disponía de un instrumento definitivo a la hora de dilucidar este tipo de cuestiones como era la sentencia del veintiséis de abril de dos mil dieciocho del tribunal de justicia de la unión europea

el órgano máximo a la hora de dilucidar el encaje en la normativa europea de la normativa de otros estados de otros rangos inferiores determina en esa fecha que los impuestos medioambientales a los establecimientos comerciales

comercial ni se constituyen ayudas de estado y categóricamente su resolución número cincuenta y dos dice que el tributo busca corregir y compensar el impacto territorial y medioambiental de la actividad de estos establecimientos habida cuenta de los flujos de circulación que provocan en la consideración número cincuenta y tres de la sentencia dice nuevamente

negativos sobre el medio ambiente una vez conocida esta sentencia del tribunal

ya parece ser que en ámbito legal el debate no existe y la respuesta es se puede establecer un impuesto de este tipo sí sí se puede establecer un impuesto medioambiental

azter dezagun lehenengoz bigarren hau aspectos ecológicos el artículo número dos de la ley que euskal herria bildu

este impuesto grava la especial capacidad económica de determinados establecimientos comerciales como consecuencia de su implantación como grandes superficies

sobre la ordenación del territorio el medio ambiente y las infraestructuras sin asumir su coste es decir buscamos aquello que supone un principio fundamental de la fiscalidad medioambiental internalizar las externalizaciones es decir que aquellos daños que se produzca en el medio ambiente también supongan un coste para aquel generan estas realidades los grandes equipamientos comerciales en realidad en esta cámara y habida cuenta de que hace muy poco hace un par de años se aprobó por unanimidad una ley sobre la ordenación territorial de los grandes establecimientos comerciales que partía precisamente de esa premisa de que generar tanto a nivel de contaminación como sobre la organización del territorio

a quien ya ha votado leyes que contienen esta premisa pero bueno a modo de recapitulación

siempre que existan razones imperiosas de interés general y el interés general considerado en esta ley es precisamente la protección del medio ambiente y de forma específica y entre otras razones el artículo cinco punto seis de esta ley a

la movilidad sostenible para lo cual propone que los centros comerciales no se instalen en la periferia los centros comerciales instalados en la periferia según

las consultoras ikertalde y ekolur basados en los estudios de la movilidad de la comunidad autónoma vasca en concreto en el año dos mil dieciséis

por ciento de los desplazamientos que se realizan para hacer compras se realizan en coche eso supone y aquí aparece reflejado en este gráfico el seis por ciento del volumen total de todos los desplazamientos en coche que se realizan en la comunidad están destinados a hacer compras y por tanto la mayoría de ellos van destinados a centros comerciales el seis por ciento de todos los desplazamientos en coche se hacen para acudir a centros comerciales lo cual

en nuestra comunidad generan anualmente treinta y seis millónes de desplazamientos en coche o lo que es lo mismo una media de aproximadamente ciento cincuenta mil desplazamientos en coche al día ciento cincuenta mil desplazamientos en coche al día para hacer compras

este tipo de movilidad hacer compras en vehículo privado cuando esas compras se pueden hacer de otra manera sostenible en los centros de las ciudades choca principios y con las leyes actualmente en vigor con cuáles pues prácticamente con todas las que hacen referencia a la ordenación del territorio

la ley general de protección de medio ambiente del país vasco que habla también de la sostenibilidad del medio ambiente urbano la estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible que habla de un modelo de movilidad integrada y sostenible

que promueve una movilidad más racional y sostenible la estrategia vasca de cambio climático que habla de eficiencia y resiliencia del territorio y por tanto no de estos modelos de movilidad

la hoja de ruta de los sectores difusos para la eliminación de los gases de efecto invernadero una normativa estatal podríamos hablar de la ley de cambio climático del pacto verde europeo del acuerdo de parís etcétera etcétera por tanto yo creo que queda absolutamente demostrado que desde el punto de vista ecológico

comerciales a través de su generación de movilidad inducida de muy alta densidad están en contra de una movilidad sostenible por tanto provocan una grave externalidad medioambiental no solo en cuanto a la congestión

normativa la perspectiva de la fiscalidad verde analicémoslo desde el punto de vista fiscal

de periferia en la comunidad autónoma vasca el cincuenta por ciento de ellos en el gran bilbao y una tercera parte en la margen izquierda

que apretándonos un poquito apretándonos un poquito la totalidad de la población de la comunidad autónoma vasca cabría físicamente dentro

estamos hablando por tanto de una realidad importante también en su dimensión física en su extensión guk proposatzen

tasas e impuestos aquello del emperador vespasiano cuando recibió el dinero de la tasa que había impuesto sobre las letrinas se lo llevó a la nariz y dijo non olet

es si con esta recaudación provocaríamos un efecto económico negativo que hiciera descompensar el efecto positivo de recibir este dinero en las arcas públicas

zerga hau ez aplikatzeko hemos visto que este impuesto se puede aplicar hemos visto que desde el punto de vista medioambiental y fiscal este impuesto se debería aplicar

va a rechazar si quiera tomar en consideración esta ley y lo hace fundamentalmente y por razones las razones que hasta el momento conocemos

del gobierno vasco para emitir dictamen desfavorable a la admisión de esta ley zer esaten digu jaurlaritzak irizpen horretan laburbilduz

empezaremos por el final la pandemia ha afectado al sector a qué sector

sí la pandemia ha afectado al comercio siendo una razón coyuntural la pandemia no habría ningún obstáculo para que si existen razones coyunturales esta ley tuviera algún tipo de disposición transitoria que hiciera entrar en vigor una vez superados los efectos de la pandemia

con una cláusula de suspensión para ponerla en vigor cuando la pandemia hubiera pasado de hecho en nafarroa durante en abril del año dos mil veinte se minoró la cuota

ante el temor de que pudiera generar disfunciones en el funcionamiento de los centros comerciales por la pandemia es decir podíamos

o podíamos suspenderla podíamos hacerlo si el problema es la pandemia la pandemia se puede digamos eludir mediante

razón la pandemia es excusa y además la pandemia no ha afectado tan duro a los grandes equipamientos comerciales se habla mucho del efecto en la hostelería se habla mucho del efecto en el comercio tenemos

a la perfección pero en realidad el impacto ha sido desigual y el impacto no ha sido igual en el pequeño comercio o en el gran comercio de hecho con los datos que tenemos disponibles según el eustat

de hecho en el primer cuatrimestre del año dos mil veintiuno las ventas se incrementan con respecto al mismo periodo

y el empleo se incrementa en un cero coma cuatro por ciento es decir en el primer cuatrimestre están creciendo en empleo y en ventas es verdad que hay una comparación con una parte del año pasado

de la pandemia pero es que si analizamos el año dos mil veinte en su conjunto el año dos mil veinte en

se creció un dos por ciento en las ventas es decir el año de la pandemia no ha sido un año de colapso para los grandes equipamientos comerciales ha sido un año desigual que no ha afectado a todos los

que le ha ido bien a la alimentación pero le ha ido también bien a muchos de los llamados a pagar este impuesto como los leroy merlin los mediamarkt quizá no le ha ido tan bien a los zaras y compañía pero no entendemos

un sector precisamente económicamente débil el que representa ese modelo de negocio por tanto la pandemia ni es una razón porque se podía dilatar la entrada en vigor

comerciales de una forma tan dura hay otra afirmación del dictamen del gobierno vasco que también me parece sumamente preocupante yo diría que hasta inaceptable

como una unidad un comercio físico amenazado por el comercio online pero está mezclando churras con merinas está mezclando realidades que no solo son distintas sino que son antagónicas a en su concepción y en su situación

iraingarria da sartzea al señor amancio ortega y al comerciante de la esquina en el mismo saco como si su situación económica y su evolución comercial hubiera sido en los últimos años diecisiete millónes de impuestos es una gota de agua en el mar de ventas y de beneficios que generan las empresas que gestionan

que a su vez son propiedad de multinacionales de inversión de fondos de inversión

este cuarto argumento lo podíamos llamar la doctrina tarzán usted sabe que tarzán decía yo tarzán aquí el gobierno vasco lo que dice yo soy listo tú eres tonto es decir yo digo las cosas no tengo que demostrarlas

punto es una forma de razonar dogmática dogmática o axiomática o lo que se pretenda axiomas en realidad son dogmas verdades reveladas que no se demuestran

entorno a eso no vamos a discutir no niega la mayor pero dice que hay que consensuarlas en orden a la coordinación tributaria y con las otras administraciones

ese consenso y ese acuerdo pero eso no significa que quede limitada la capacidad de este parlamento de tomar la iniciativa y de imponer en vigor leyes en el marco

que existen y están reconocidas por nuestro ordenamiento yo no sé si el señor rementeria cuando bajó los impuestos de sociedades a las empresas en lo más duro de la crisis de la covid o cuando hizo cambios fiscales para atraer a brokers a bilbo se vino a este parlamento a pedir cuentas o no vino él hizo lo que creyó oportuno y punto yo creo que este parlamento

la reflexión también con otras instituciones tanto municipales como forales con competencias en el ámbito fiscal pero eso no significa que no tenga la capacidad de tomar

la proposición de ley presenta inexactitudes conceptuales en el articulado y tanto la exposición de motivos como el propio articulado contiene un planteamiento incorrecto del sistema tributario esto es un poco lo que decía antes la doctrina tarzán que de qué me estás hablando es decir contiene incorrección un planteamiento incorrecto

y cómo debatimos si no me dices lo que estás tratando de argumentar

tienen inexactitudes y cosas que están mal cuáles seguirá en el próximo capítulo

que promulga este gobierno a quién preguntamos para saber cuáles son las inexactitudes

porque se remiten a la explicación de voto por tanto no es solo que se bloquee la admisión a trámite esta ley es que se niega el debate se niega el debate

ya habéis llegado a un nivel de superioridad y de soberbia autoproclamada

posiblea izango dela vuelvo a retomar unas declaraciones del señor gentiloni el comisario de economía de la unión europea no en el marco de la anterior conferencia la que he mencionado al inicio de mi intervención sino en respuesta a una pregunta formulada en el parlamento europeo

bien diseñado desempeña un papel importante en el apoyo a la transición ecológica los impuestos medioambientales contribuyen a proporcionar las señales y precios correctos y los incentivos adecuados fomentan un consumo menos contaminante y dice literalmente que el principio de quien contamina paga está consagrado en los tratados de la unión europea concretamente en el artículo ciento noventa y uno punto dos como me parecía un principio poco coloquial eso de que el que contamina paga un poco pasa así como entre amiguetes he ido a mirar

literalmente se dice que quien contamina paga y por tanto yo creo que quien desarrolla una actividad comercial

que obliga a su usuario a utilizar de forma preferente el coche privado que provoca treinta y seis millónes de desplazamientos con las consiguientes emisiones

afección a la salud de las personas genera una externalidad que tiene que estar tasada mediante el ejercicio de la fiscalidad

por eso presentamos una ley que creemos bien estructurada que está basada en leyes ya en vigor que igual nos hubiera gustado hacerle alguna cosa de otra manera pero que sabiendo que esto podía tener el peligro

se ha basado en las leyes de las comunidades donde ya está vigente donde está vigente y aprobado

como a otros y a ver dónde sacamos una ley y vamos a ver aragón qué tiene no no lo hemos hecho precisamente

una ley blindada y una ley que ya ha pasado el cedazo de los tribunales es una ley que nos da solidez y seguridad jurídica

sólido y blindado jurídicamente susceptible de mejoras por supuesto de precisiones en el trámite legislativo

y tres disposiciones finales precisa porque es preciso el ámbito que se tiene que regular y que respeta el papel de las diputaciones y de otras instituciones que recoge en varios artículos disposición final para ser armónica con el sistema tributario y la arquitectura

se incardina además con otra iniciativa sobre la fiscalidad del comercio electrónico paralela a esta que debatiremos en comisión amaituko dut la fiscalidad verde juega un papel creciente los centros comerciales son susceptibles de ser tasados mediante una fiscalidad verde la instauración de impuesto medioambiental cumple la normativa estatal y europea y está dentro del marco competencial

no quieren ni debatirlo en temas fiscales están a la derecha del diario el país y de la comisión europea están a la derecha de biden cuando piden subida de impuestos a las empresas y aumento de los estímulos públicos están a la derecha de la ocde cuando habla de impuestos verdes impuestos al capital y al patrimonio y no pasar la factura de la crisis a los trabajadores

se ponen el disfraz verde pero a la hora de la verdad asoman la patita de sumisión a las grandes empresas y a los grandes empresarios eskerrik asko

oír al señor casanova que diga que se niega el debate en esta cámara es una curiosa frase viniendo de ellos ellos a problemas complejos soluciones sencillas ese es el resumen de esta propuesta de bildu que no tiene efectivamente ni pies ni cabeza

realmente es un disparate que no ayuda en nada a nuestro sistema productivo es únicamente si queremos apoyar al pequeño comercio y al mediano hemos de potenciar sus virtudes pero no podemos tratar de hundir mediante una guerra impositiva a los centros comerciales en general el árbol señores de bildu no les permite ver el bosque por eso son inútiles imposibles de aplicar y por supuesto de hacerlo nos esperaría ruina y más ruina en vox somos amigos del comercio ustedes son sin duda alguna su enemigo tanto del comercio como de la libertad

muchas gracias señora presidenta señorías miembros del gobierno propone el grupo parlamentario eh bildu un impuesto medioambiental sobre los grandes establecimientos comerciales

en enero del año dos mil veinte y ahora se ha recuperado para someterlo a consideración de esta cámara

sobre todo parte de la base de que los grandes establecimientos comerciales contaminan mucho

son ricos y poderosos contaminan mucho sobre todo porque la gente tiene que ir en coche claro

cualquier establecimiento sea una universidad sea un centro de trabajo etcétera que se encuentre en el extrarradio o que la gente tenga que acudir en transporte público o en coche también

con lo cual hombre yo creo que aquí se parte de una base yo creo

autocalifique como verde va a ser un impuesto verde un impuesto verde

para incentivar nuevos comportamientos en este sentido más ecológicos según el proponente hombre habría quizá otros mecanismos nosotros vamos a votar hemos votado en contra de la toma en consideración por tres tipos de razones jurídicas económicas y de oportunidad primero por razones jurídicas

y lo del planteamiento incorrecto el modelo tributario hombre yo creo que aquí también porque

gestionados por las diputaciones forales otros que están gestionados o que mejor dicho que en este caso se crearían por la comunidad autónoma etcétera

a a ser posible con la presión fiscal general por lo tanto sí que yo creo que sacar un impuesto de estos sin haber procedido a unos estudios previos

que no es del todo el más correcto de lo que es el modelo tributario vasco además se solapa con otros impuestos se solaparía con otros impuestos porque claro leo el artículo uno punto dos de la proposición

este impuesto grava la especial capacidad económica de determinados establecimientos ya que producen efectos negativos sobre la ordenación del territorio del medio ambiente y las infraestructuras sin asumir su coste

un coste sí que se está asumiendo socialmente por parte de esas empresas en segundo lugar por razones económicas cuando se suben los impuestos quién lo acaba pagando cuando se sube un impuesto en estas condiciones

se acaba repercutiendo el coste hasta el consumidor final con lo cual este impuesto lo que va a hacer es perjudicar al consumidor final porque lo que va a hacer es aumentar el precio final que tienen que pagar los consumidores por servicios básicos por cierto que las grandes superficies serán servicios y serán sobre todo productos básicos

del iva por cierto que además es el impuesto más regresivo que hay que por cierto ustedes han criticado bastante en esta cámara por lo tanto yo creo que esto aquí tampoco se sostendría y finalmente por razones de oportunidad

son los autónomos estos poderosos ricos a los que hay que gravar pues yo creo que no yo creo que lo que hay que hacer es

es el peor momento además para plantear una subida de impuestos en estos momentos en los que además

se atisba una oportunidad para iniciar la senda de la recuperación y además que en las grandes superficies ya se están pagando bastantes impuestos insisto es que se paga el iva se recauda también se paga el iae

es decir leyendo la propuesta lo que parece que busca

porque no están asumiendo el coste que experimenta su actividad económica hombre

creadoras de empleo y también dinamizadoras de la economía en fin por estas razones y alguna más tampoco voy a aburrir a sus señorías nuestro grupo ha votado en contra de la toma en consideración muchas gracias señora presidenta

favorablemente a la consideración decir que bueno y no es por entrar en debate pero más que sancionar a las grandes superficies

de la incidencia medioambiental que supone su actividad en cualquier caso

la toma en consideración de la proposición de ley lo que permitiría sería una reflexión respecto al modelo comercial y también respecto a las incidencias medioambientales que este supone en lo que respecta fundamentalmente al vehículo privado y al acceso

sí que es verdad que esta proposición de ley no es sin duda una panacea ni va a resolver lo que tiene que ver con el modelo

estableciendo en nuestro país ni tampoco va a ser una panacea en relación con el uso del vehículo privado en cualquier caso sí que creemos que de cara a favorecer el debate de cuestiones tan relevantes negar la toma en consideración

salvo que se esté absolutamente en contra de lo que tiene que ver con reflexiones de un cariz tan relevante sí que creemos que en lo que tiene que ver con la redacción y de ahí que quisiéramos poder plantear enmiendas a la proposición de ley

que nosotros modificaríamos como es la tasa de gravamen que creemos que tal y como se ha fijado en el texto probablemente no llegaría a alterar los comportamientos

de la base imponible y también creemos que se requiere cuando se proponen este tipo de cuestiones hacer una reflexión pero

analizar el grado de elasticidad de la proposición de ley de su aplicación en cualquier caso ya digo es una pena

en su trámite a la vista del sentido del voto en cualquier caso

en esta línea y procurando alterar el modelo comercial y de consumo en este país porque es la única forma también de alterar los paradigmas medioambientales

gracias presidenta consejeros consejera buenos días

de nuestro derecho reconocido en el reglamento de esta cámara respecto a las proposiciones de ley los socialistas vascos intervenimos en este turno de explicación de voto igual que el resto

y los socialistas vascos hemos votado en contra de esta iniciativa por los siguientes motivos primero porque compartimos el criterio desfavorable del gobierno vasco cuando manifiesta

no solo sería contradictorio con un modelo tributario vasco basado en el acuerdo

sino que también podría producir en este momento disfunciones en la política de protección al comercio un sector que en la actualidad se encuentra afectado por la pandemia de manera directa en segundo lugar esta circunstancia se basa tanto en los índices de venta de dos mil veinte

en lo que llevamos de año los socialistas vascos compartimos con diversas analistas que el impuesto

para evitar o al menos minimizar el impacto que determinados establecimientos comerciales causan en el territorio y en el medio ambiente

y los socialistas estamos a favor del modelo de ciudad compacta y la proliferación de formatos comerciales ubicados fuera del entramado perdón

constituyen un atentado claro contra ese modelo de ciudad compacta

sino que también desde la perspectiva europea se hace una apuesta de esta tipología

la unión europea plantea una clara vinculación entre un modelo de ciudad compacta y la protección del medio ambiente y de ahí que consideremos adecuado encuadrar este impuesto

en el marco de una legislación autonómica como tiene esta comunidad que a través de un texto refundido regula los impuestos medioambientales

también creemos que se hace necesaria la intervención del órgano de coordinación tributaria de forma previa

de este impuesto intentando buscar el consenso y el acuerdo interinstitucional

desaconsejan el establecimiento de una medida que pudiera perjudicar la recuperación de un sector con problemas estructurales prepandemia y que ahora se han visto agravados

habiendo otros problemas en lo que a la fiscalidad comercial se refiere que tienen una perspectiva mucho más global que requieren un abordaje con un enfoque transnacional porque como decía yo misma en el debate de dos mil diecinueve el gran adversario del comercio está fuera de nuestras fronteras y despejadas hoy algunas dudas jurídicas que entonces los socialistas vascos teníamos en dos mil diecinueve entendemos que la imposición a los grandes establecimientos comerciales debe implantarse en euskadi

a la activación económica de este sector encuadrándola en la fiscalidad verde vasca

interinstitucional que en materia tributaria no son propio necesitamos un sistema bien diseñado y en eso estamos los socialistas vascos nada más gracias

desde el partido nacionalista vasco siempre hemos defendido la relevancia del sistema tributario trascendental para sostener

y dicho sistema fiscal debe ir obviamente adaptándose a las nuevas realidades como es la transformación energético ecológica e incluyendo por tanto elementos de fiscalidad ambiental y este es precisamente uno de los compromisos que constan en el programa de gobierno

pero no con medidas como la que eh bildu nos propone hoy en este debate autodenominada verde y no precisamente con el concepto de verde que tiene

de ahí nuestro voto en contra no por el momento temporal la citada revisión fiscal no debería entrar en vigor este año porque

un incremento positivo en general y con una figura impositiva como la que nos proponen ralentizaría

estableciendo ahora debates en todos estos foros internacionales pero no solo es nuestra opinión sino también es una conclusión que comparte

pero lo dice la ocde en su último informe de veintisiete de mayo de la semana pasada

debe ejecutarse solo cuando la recuperación económica esté firmemente encaminada segundo no porque también es la opinión que comparte la comisión de expertos

concretamente la propuesta número noventa y siete que propone eliminar estos impuestos autonómicos sobre los grandes establecimientos y no es solo cuestión de temporalidad que ya lo comentaba el señor casanova

o de las opiniones de los expertos y organismos internacionales que obviamente son relevantes sino

es porque este impuesto se queda lejos de alcanzar el objetivo aparentemente perseguido está claro que estos impuestos deben buscar otros objetivos y no la suficiencia financiera

establecimientos comerciales en concreto lo hace ayuda a fortalecer la competitividad del sector comercial ayuda a minimizar el impacto medioambiental

encareciendo la estructura de costes de los grandes establecimientos comerciales con ánimo proteccionista

no son más eficientes otro tipo de medidas que puedan adoptar los órganos competentes por ejemplo en el ámbito sustantivo lo más fácil es crear un impuesto pero este en concreto cumple con alguno

a que estos grandes operadores buscaran ubicaciones más próximas al centro de las ciudades

por la tipología de productos que venden espacios más grandes como por ejemplo las ventas de vehículos

sí tengo la sensación que es más bien una figura especialmente recaudatoria con la bandera medioambiental un bienqueda

no se corrige con un impuesto como el presentado nuestro grupo entiende que este impuesto no generaría una acción positiva ni cambiaría la acción de los grandes establecimientos en pro del medio ambiente

las empresas asociadas asumen ya compromisos medioambientales como la reducción de emisiones

a través de la compra de energía eléctrica de origen renovable de la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos o de la integración de flotas de vehículos de transporte con distintivo ambiental la implantación de este tributo no modificará por tanto la conducta de los agentes económicos hacia prácticas más sostenibles cuando además

dichas inversiones más sostenibles por tanto creemos que en este momento debemos impulsar otras medidas en el ámbito sustantivo ya se hizo en el dos mil diecinueve en este parlamento

y también las vemos en el trabajo del departamento de desarrollo económico por ejemplo

marco ambiental que establecerá las prioridades del gobierno vasco en materia de medio ambiente y que tendrá como eje vertebrador el pacto verde europeo cuyo espíritu se ha trasladado al contexto vasco

como saben es una sociedad pionera en el compromiso con el desarrollo sostenible el respeto al medio ambiente y la estrategia contra el cambio climático y este grupo parlamentario y el gobierno vasco trabajan desde la convicción de que la transformación energético ecológica supone también la oportunidad para nuestro futuro

eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi el periodo la regla estoy mala estoy en esos días me ha bajado

son cosas de mujeres a ti qué te pasa tienes la regla y así toda la vida

unos siete años de nuestra vida la regla es eso de lo que no se habla ese tampón que nos venden en funda de chocolatina la compresa ultraplana que nadie notará cuando llevas

a escondidas para contener el desestabilizador síndrome premenstrual

y que según algunos nos convierte en inestables emocionalmente irritables e incluso violentas

ha servido de excusa para defender que somos incapaces de hacer casi cualquier cosa desde batir mayonesa a estudiar en la universidad estos últimos párrafos son del artículo elogio de la regla que público pikara magazine en dos mil once gaur

desde mi grupo parlamentario desde elkarrekin podemos izquierda unida también queremos traer debates y hablar de la política de nuestros cuerpos desde el feminismo desde nuestras cotidianidades nuestro ciclo

y es una parte importante de nuestra experiencia corporal y psicológica la experiencia que a día de hoy según el eustat vivimos

y así hoy vamos a hablar de menstruación y vamos a hablar de pobreza menstrual por aclarar conceptos consensuar de qué estamos hablando y desterrar algunas ideas preconcebidas esta proposición no de ley no trae un concepto que nos hayamos inventado nosotras ojalá fuera así pero bueno resulta que desde organismos internacionales y desde la agenda de los derechos humanos ya existe literatura

lo que no existe lo que no existen son políticas públicas

que pueda haber cierto desconocimiento sobre el término por ser bueno pues eso quizás la primera vez que se debate con un enfoque central en este parlamento aunque mirando la hemeroteca hemos visto como uno de nuestros compañeros de la legislatura pasada

y salió adelante años de dolores dificultades para quedarse embarazada o reglas insufribles

y eso es la endometriosis algo que ha tenido que abordarse desde la patología

y aquí quiero seguir desmontando algunas ideas preconcebidas como que haya que abordar este tema desde un enfoque asistencialista centrado exclusivamente en el acceso de colectivos vulnerables a productos relacionados con la higiene menstrual

limitar una proposición no de ley a ese tema concretamente pues bueno sería cuanto menos

y entraría dentro de esos mecanismos de control que establecemos muchas veces para las personas en situación de vulnerabilidad además que no coloca en el centro la autonomía de las mujeres y su derecho a la salud entre otras muchas cuestiones

que proveen de productos de manera urgente o inmediata y

esto es una cuestión que la verdad que ponemos en valor también pero debemos colectivizar el impacto que supone en nuestras economías y vidas

que se aplica a estos productos o la huella ecológica que dejan frente a estas percepciones desde elkarrekin podemos izquierda unida

y la salud menstrual desde un enfoque de derechos desde un enfoque de igualdad y un enfoque de salud pública y educación sexual integral

lo que estamos haciendo es invisibilizar las formas de machismo de violencia machista que experimentan nuestros cuerpos

por aclarar otro punto usamos a diario otros marcos conceptuales como el de pobreza infantil o pobreza energética como instrumentos

que contribuyen a la transmisión de la pobreza intergeneracional o para llamar la atención sobre aspectos que no necesariamente tienen que ser abordados desde la protección social y esta función es la misma que cumple en esta iniciativa el concepto de pobreza menstrual orduan zein da guretzako gaurko helburua

económico y político que se ve atravesado por la raza por el género por la orientación sexual por la clase social la localización y todos aquellos pequeños detalles que nos hacen vivir en nuestro cuerpo tal y como vivimos esta frase está sacada

esta autora habla precisamente de esta construcción política envuelta en varios mitos el mito el primero es el mito

sobre el que se asienta la feminidad pero en una sociedad

físicos mentales y anímicos que conlleva el segundo mito es el de que tener la regla lleva aparejado siempre dolor y sufrimiento dolor y sufrimiento lo normal

y además así nos lo han recordado desde la religión

y esto hace esto viene a hacer que nuestra salud empeore poco a poco y se cronifique el tercer mito es el de que es posible deseable y esperable socialmente que no mostremos vulnerabilidad con este tema sobre todo para que no tenga repercusiones laborales en el ámbito laboral

se ven siempre influenciadas porque vivimos en una sociedad que nos niega el derecho a cuidar de nuestro cuerpo

si no podemos con todo y ahí el no poder con todo la tiranía de

con las tareas y privilegios que tenemos repartidas y atribuidas socialmente hay otro cuarto mito que es el de que

y que así se legitima el doble sesgo cuando mostramos rabia cuando damos nuestra opinión cuando nos manejamos en el conflicto porque hay un relato preconcebido que permite minimizarnos menospreciar nuestros aportes y hacernos dependientes de los cambios hormonales y el quinto mito

es de antiguas porque es un efecto perverso la ciencia y el desarrollo farmacológico en el ámbito anticonceptivo ha sacrificado más de lo debido el estudio de los impactos sobre el ciclo menstrual de los métodos

señalándonos como factores que contribuyen a la vulnerabilidad social

que encierra la ignorancia del hecho menstrual esto es lo que denominamos pobreza menstrual como concepto político es una problemática

que está afectada por el consumo por la educación la política la sanidad el acceso a equipamientos sanitarios la existencia de construcciones sociales

fundamentalmente es una cuestión de salud de derechos y de igualdad

en el enfoque de derechos nos obliga a actuar teniendo en cuenta también el impacto que genera nuestra inacción

de factores generadores de pobreza menstrual qué derechos lleva aparejados desde qué ámbitos es necesario actuar

esta proposición que traemos hoy entronca con la meta cinco punto seis de la agenda dos mil treinta en la que nos hemos comprometido y en la que este gobierno autonómico

tiene un compromiso también coincide con un eje desplegado dentro de la iniciativa generando equidad de naciones unidas el enfoque de la salud de la salud pública desde este enfoque no solo porque

porque está directamente relacionado con la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de los sistemas de salud y en la planificación estratégica

hacia sociedades resilientes saludables y no patologizantes salud

es una cuestión de salud pública y ahora más que nunca está vigente en este debate con el impacto que ha tenido la covid que el número de personas por debajo del umbral de la pobreza

muchas familias están dejando de percibir ingresos y tienen graves dificultades para cubrir necesidades básicas incluido el acceso a productos de higiene menstrual

etapa del instituto pues eso cuando tenías que levantarte la incomodidad de preguntar o pedir permiso

el fenómeno de la primera menstruación yo creo que por generación todas hemos vivido quizás ahora eso está un poco superado

pero bueno y sobre todo igual en el propio auto odio que nos infringíamos a nosotras mismas y que eso es como un entrenamiento que nos hacemos para incomodar nuestros cuerpos nos acostumbrábamos a ese dolor a pasar muchas veces lo reprimíamos a fingir que no pasaba nada esas cinco horas que estabas sentada

y dedicabas un gran espacio mental y yo creo que todavía se dedica a que no se note en resumen que lo normal es no estar a gusto y esto pues bueno parecen anécdotas pero yo creo que todas entendemos perfectamente de qué estamos hablando

y eso solo pasa por una política educativa en la educación reglada

y cómo deconstruir los mitos cambiar estereotipos fomentar el empoderamiento de las niñas y adolescentes para sobre todo para que el acceso a la información y la generación de conocimiento en torno a la salud menstrual y la higiene sea atendida

el enfoque de políticas públicas estratégicas aquí el autocuidado o el cuidado comunitario puede ser una respuesta inmediata pero debe siempre venir acompañado desde la colectividad

que le dé al cuidado el valor social y estratégico que tiene para la sostenibilidad de nuestras vidas y en este caso

y porque si no ponemos el cuidado en el centro las mujeres y los cuerpos que se empobrecen en materia de salud son las nuestras pero también en materia sanitaria y generan desigualdades económicas por el acceso también a trabajos más precarios no queremos quedarnos atrás yo creo que hoy es una oportunidad aparte de debatir por primera vez este tema de poder decir que seguimos siendo pioneras

de pequeños logros o de pequeños pasos y esto requiere seguir abriendo caminos tenemos ejemplos en otros países y en otros territorios como escocia en nueva zelanda aquí cerca pues tenemos en iparralde

con la iniciativa de que toda administración pública y espacio comunitario del ámbito local

esto podría ser una experiencia piloto sabemos que en esta ocasión no ha salido adelante pero podemos seguir trabajando en ello y nosotras seguiremos trabajando en ello y sumarnos a los esfuerzos también en el ámbito estatal no queremos ni debemos quedarnos rezagadas

ni seguir silenciando todo lo que tiene que ver con la regla esta es una proposición que puede suponer un primer paso en una reparación también histórica que entronca con demandas

como que el conocimiento de las mujeres sobre todo lo que nos ocurre a nosotras y a nuestros cuerpos se ha valorizado igual que el conocimiento que es producido desde la mirada

o que la transversalidad de género sea real y sea aterrizada en políticas concretas y que pongamos el cuidado en el centro pero de verdad gugatik

sí gracias presidenta debatimos en este punto sobre el impulso a las políticas que aborden la pobreza menstrual la pobreza es fenómeno multidimensional que se manifiesta

en la sociedad en que vive esa persona siendo la pobreza menstrual una de esas carencias

sino también la dificultad de acceso a las instalaciones necesarias para higienizarse correctamente

la pobreza menstrual se deriva de una pobreza económica cubrir las necesidades de higiene en todas las adolescentes es un reto

fundamental internacional de derechos humanos dignidad y salud pública que se incluye en cuatro de los

dos mil treinta es innegable que la ausencia de recursos económicos suficientes

y al acceso a bienes materiales que permiten llevar una vida de calidad pero la tipología de la pobreza suele venir clasificada más en función de una severidad y de su relatividad en el entorno en el que se vive o en función de los colectivos a los que les afecta en la privación de determinados bienes

consideramos que la pobreza debe abordarse de forma integral no por parcelas en función de la privación de determinados bienes en aquellas personas que

es decir categorizar la pobreza en base al acceso a determinados bienes relativiza su gravedad y la resuelve parcialmente eso sí pero tiene que abordarse el problema estructural de fondo y en las condiciones de vida de las personas en general

pueden tener una vida digna y para ello los recursos deben destinarse a planteamientos integrales para salir de la pobreza por eso

u otras aunque es cierto que en determinados momentos evidentemente se tienen que adoptar medidas que puedan determinados suministros de alimentación suministros energéticos productos de salud la privación de productos relacionados con la salud presentes en muchos hogares en situaciones vulnerables y que junto con los suministros del hogar constituyen los bienes que necesitan

en un hogar que vive en pobreza se toman decisiones difíciles a la hora de gastar el dinero disponible las mujeres pobres tienen que elegir entre comprar arroz o comprar tampones o poner la calefacción

es la pobreza en general la que les impide vivir en condiciones dignas mi grupo parlamentario consideramos que este debate se debe diferenciar también del debate de la tasa rosa que debe priorizarse por contar con un ámbito de actuación

y en este debate y su abordaje de forma integral es en el que centramos nosotros el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista nuestra enmienda a la totalidad inicial y luego también se ha plasmado dentro de la enmienda transaccional

llegado con el grupo elkarrekin podemos como ningún otro grupo parlamentario ha presentado enmiendas en esta iniciativa evidentemente la transaccional se ha realizado exclusivamente entre los grupos enmendantes señalarán los diferentes grupos su opinión en esta materia

son bienes de primera necesidad para garantizar la salud y no un lujo y por tanto deben de tener un

y también tiene que tener en cuenta que además de los productos de higiene femenina no tienen por qué tener precios diferentes productos de edición femenina que en muchas ocasiones suelen ser también más caros en todo caso

sin recursos es una medida que puede llevarse a cabo así como otras parciales que

la consideración como un bien esencial de estos productos creemos por tanto que reducir el debate a la pobreza menstrual parcializa

son esenciales para crear una sociedad igualitaria y justa las mujeres

por qué pagar más por productos idénticos solo porque se destinan a las mujeres con otros formatos específicos para mujeres pero tampoco tenemos que pagar

en productos de primera necesidad porque son productos que necesitan utilizar el cincuenta y uno por ciento de la población es por eso por lo que en esta iniciativa en nuestra enmienda

a la totalidad tuvimos en cuenta tuvimos en cuenta este enfoque integral

estas cuestiones dentro del plan de lucha contra la pobreza y también la referencia

a la tasa rosa y además nosotros en nuestra enmienda a la totalidad tuvimos en cuenta también que

adecco existen pocos datos sobre las posibles dificultades para adquirir productos

recursos y eso se ha tenido en cuenta se plasmó en nuestra enmienda a la totalidad y se ha plasmado en la enmienda

a la que hemos llegado al acuerdo con el grupo elkarrekin podemos el grupo nacionalista vasco y mi grupo los socialistas

y dentro de esta enmienda transaccional lo que se insta es a realizar un estudio específico precisamente de esta cuestión que luego sirva para poder elaborar un diagnóstico que contenga recomendaciones y orientaciones

se incorpore a la planificación ordinaria que se lleva a cabo y se tenga en cuenta respecto a esta

ámbito de la pobreza en general y además que se tenga

iniciativas y apoyar todas las iniciativas estatales que impliquen la reducción o gratuidad en el coste de los productos

como la gratuidad completa así como realizar un informe sobre el alcance e incidencia de la llamada tasa rosa

y en el ámbito estatal por nuestra parte desde luego agradecer a la señora gonzález

el trabajo realizado que ha permitido poder llegar a esta enmienda transaccional que creo

importantes y que abarca el problema que hoy hemos debatido
hoy aquí en este pleno nada más y muchas eskerrik asko sánchez andrea

así decía este primer estudio sobre la pobreza en euskadi el plan integral de lucha contra la pobreza así concebido solo tiene sentido si se aborda desde una perspectiva global

con unas políticas sectoriales que aborden todos los aspectos tanto educativos como sanitarios laborales culturales asistenciales de vivienda etcétera del problema

del plan integral pero dentro del conjunto de medidas estratégicas que deben adoptarse se le encomienda como objetivo básico

unidad familiar y es que como decía desde nuestro grupo es así como entendemos la pobreza desde la más amplia de sus concepciones

que aborden todos sus aspectos siendo totalmente transversal eta hortik abiatzen gara gaurko ekimenaren defentsan ekimen originalera joanda

ez dekien kolektiboentzako laguntzak be bai y es que por ejemplo en el programa vasco de recuperación y resiliencia euskadi next ya se contemplan también

además de nueve mil trescientos nueve millónes para ayudas fondo de ámbito de exclusión

cámara que bienvenidas sean gaurkoa bezalakoa el gobierno vasco está trabajando para acompañar a estos colectivos más vulnerables en su lucha por conseguir una vida digna y ese compromiso del gobierno vasco también lo podemos encontrar en el propio programa de gobierno

el compromiso de reforzar las actuaciones de prevención y abordaje de las personas sin hogar pobreza en situación de pobreza energética y de otras situaciones de pobreza

situaciones de discriminación múltiple o carecen de red de apoyo social y todo ello para las personas más vulnerables incluidas las mujeres porque la pobreza menstrual

y es por eso como decía que consideramos inaceptable la aplicación de la llamada tasa rosa dicho breve y superficialmente tasa que se les aplica a los productos de higiene femenina desde nuestro grupo entendemos que todas las instituciones competentes deberían elaborar en colaboración un informe sobre la existencia alcance e impacto de la denominada tasa rosa es decir un informe de las iniciativas y acciones políticas e institucionales en todas las áreas competenciales

abarcando un amplio análisis de los productos afectados y de su precio con el fin de que permita llevar a cabo la eliminación o reducción de la denominada tasa rosa y que los productos ahora recogidos por esta tasa pasen a ser considerados productos básicos y así lo hemos querido trasladar en nuestra enmienda inicial y también como he dicho en la transaccional que hemos conseguido con el grupo elkarrekin podemos instamos al gobierno vasco a que elabore este informe para conocer la situación que abordamos hoy pero también instamos al gobierno del estado a que lo haga precisamente a nivel estatal

amplia sobre esta cuestión y es que además no debemos olvidar

así lo hemos pedido los y las representantes del partido nacionalista vasco en distintas instituciones

hasta en el propio congreso de los diputados con lo cual esta cuestión a nuestro grupo por lo menos nos suena

podemos considerar oportuno que se le inste al gobierno vasco a realizar este informe de conocimiento y a apoyar todas las iniciativas que favorezcan a eliminar o disminuir la tasa rosa

como en el texto que hemos acordado pero si las instituciones verdaderamente competentes para ello no lo hacen pues de poco puede servir lo que pidamos

gracias señora presidenta buenos días a todos una

a la que su economía no le permite adquirir productos de primera necesidad para su menstruación no tiene pobreza menstrual es pobre en el sentido estricto de la palabra

es pobre a pesar de que el gravamen encima de estos artículos es del veintiuno por ciento y de eso ustedes no han dicho nada

y que todos hemos visto además que carece de sentido desde vox nos negamos a hacer bandera de una compresa pensar que repartiendo tampones se reduce la pobreza eso es demagogia

de podemos nos condena con un recibo de luz el doble de caro por ejemplo

pero no por pobreza menstrual sino porque son productos de primera necesidad repito igual que lo son otros muchos

vayan por ejemplo a las colas del hambre y verán lo que es pobreza y no precisamente menstrual pobreza a la que condenan con sus sablazos las mujeres sometidas a la hambruna sufren pérdida del periodo menstrual no sé si lo sabían por eso señorías de podemos harían mejor en atacar las causas de las colas del hambre de la pobreza estomacal y vital en lugar de andar bailando al son irene

natural de cada veintiocho días tratando de tapar la principal consecuencia de sus

lo que necesitamos es trabajo trabajo y medios para atender el sustento y la dignidad de los miembros activos de la sociedad para que todos puedan ganarse su pan y el de sus hijos el resto se solucionará solo menos cuentos y más política útil sin embargo desde vox no entendemos cómo traen este tema al parlamento vasco

hagan memoria o acudan a la hemeroteca les recuerdo que en dos mil diecinueve firmaron un acuerdo de gobierno en el que era uno de los puntos más importantes no sé si lo recuerdan pero año y pico después han firmado unos presupuestos generales del estado y qué curioso no han incluido este punto

todos aplaudimos un iva superreducido de estos productos pero no se equivoquen no lo hacemos por ser feministas sino por cuestión de justicia social igual

leche para bebés y muchos más hablan de las mujeres como si fuéramos un todo único como si no hubiera diferentes mujeres con diferentes formas de pensar

íntimo yo lo que creo es que cada mujer viva el momento menstrual como le dé la gana no como nos digan todos ustedes para unas será un momento íntimo para otras pues será un cambio de humor para otras un momento de liberación

libre para vivir y sentir ese momento como decida vivirlo y no como la izquierda sectaria nos obligue

por tener la regla nos quieren imponer problemas que no tenemos la gran mayoría de las mujeres y para aclarar ya por último lo de la tasa rosa que he visto en la enmienda del partido nacionalistas si hablamos de la tasa rosa también se debería

según estudios de diversas marcas y compañías estudios repito cada sexo padece el aumento de precios en función del mercado y su demanda y no por ser de un sexo u otro

pero por el contrario la ropa femenina es mucho más barata que la masculina los fabricantes y distribuidores marcan sus directrices en la valoración de los precios en las leyes de la oferta y la demanda más allá de cualquier discurso político sea rosa o azul

es vergonzoso cómo pretenden utilizar la pobreza y la situación de los más desfavorecidos con fines propagandísticos para sus ideas políticas

sailburuak legebiltzarkideok egun on nosotros vamos a apoyar la enmienda de transacción suscrita por

me gustaría realizar también algunas consideraciones sobre este tema

económica y conlleva la dificultad de

femenina así como la dificultad de cubrir ciertas necesidades en el ámbito de la higiene femenina pero también tiene que ver con otra cuestión que me parece importante a la que no se le ha hecho demasiada referencia me ha parecido en las intervenciones pero sí en el texto que se ha transado que es todo lo que tiene que ver con las medidas de promoción de la salud y educación sexual

salud pública y en ese sentido creo que hay que hacer un esfuerzo también en todas las medidas que tienen que ver con la promoción de la salud yo sí tengo que decirle señora gonzález que creo que no hay tantos mitos en relación a esta cuestión yo por lo menos en los ámbitos en los que me muevo todo lo que tiene que ver con la

naturalidad y desde luego quiero decir que las mujeres podemos tener momentos complicados

más agujetas de las normales por lo tanto yo creo que también es importante que estas cuestiones las tratemos con normalidad

se tratan con absoluta normalidad y además creo que tiene que ser así en relación a la

que se han acordado poniendo deberes al gobierno vasco alde batetik

gure eskumenak ikusten baditugu me parece bien plantearle al gobierno central no somos competentes que pueda rebajar

como también me puede parecer bien y en este sentido creo que nosotros ya impulsamos en este parlamento la rebaja por ejemplo del iva de las mascarillas del veintiuno al cuatro por ciento que finalmente

ley el diecisiete de noviembre del dos mil veinte esto sí que también era un sinsentido y creo que el gobierno central en esta materia anduvo tarde y finalmente se redujo

del veintiuno al cuatro por ciento de las mascarillas quirúrgicas no en las mascarillas efe efe pe dos

y creo que como puede ser importante hablar de estas cuestiones de la pobreza menstrual pero también creo que hay otras cuestiones que tienen que ver con la pobreza y que también inciden

las mujeres especialmente como por ejemplo es el sector de las peluquerías de la estética de las barberías que también no tiene sentido mantener un tipo tan alto de iva en el veintiuno por ciento porque

muchas personas especialmente el colectivo de personas mayores que tienen que ir a la peluquería por necesidad porque tienen dificultades

o que la estética también puede estar ligada o la estética con también problemas incluso en muchos casos

cuestiones por lo tanto también tengo que decir que igual que hablamos de que es injusta la pobreza menstrual y que hay que adoptar y arbitrar las medidas necesarias para atajarla también creo que aunque no sea competente bueno pues como aquí hemos instado a que se rebaje

hemos hablado de la tasa rosa nosotros tampoco tendremos ya anuncio ya ningún inconveniente en proponer una iniciativa concreta para la reducción

estético y de las barberías del veintiuno al cuatro por ciento lo hemos hecho recientemente también en el congreso de los diputados y es una iniciativa que digo que

en este sentido son tanto las empresas como

como si fuéramos unas caprichosas por necesitar

o compresas nos están robando a la cara encima podríamos hablar en algún otro momento sobre el tipo de producto que se está vendiendo muchas y muchas investigaciones han demostrado que se siguen utilizando

destruyendo la flora vaginal

los productos que nos están metiendo también en estos productos de primera necesidad que creo que también

las culturas los estigmas y los tabús que se crean en torno a la menstruación a los ciclos vitales

creo que evidentemente estemos en ámbitos culturales sociales diferentes se vivirá se hablará de maneras diferentes pero de eso a pensar que hoy en día vivimos con una normalidad total la menstruación y sobre todo en las edades más tempranas me parece que es no ver y no realizar lo que está ocurriendo en las escuelas y por eso

a la transaccional y que habla de ello creo que hablar de educación sexual hablar de educación menstrual y hablar de cultura menstrual es muy importante y por ello y por la importancia que se le está dando a investigar realidad que tenemos en la comunidad autónoma vasca que sí hay investigaciones que nos enseñan las diferentes fases de la pobreza las diferentes situaciones pero no estamos hablando de esto creo que es muy importante y por eso nosotras también desde euskal herria bildu votaremos a favor de la

saquen sus rosarios y sus chequeras de nuestros ovarios eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea

no es fácil hay momentos para el desacuerdo y hay otros momentos para el acuerdo también

y a mí me gusta porque veo que hay cuestiones que

llegamos casi todas a unos acuerdos mínimos y a mí que este tema sea la primera vez que se debate en este parlamento y hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo

de otros partidos que van a votar a favor pues es muy importante

para nuestra sociedad y aterrizándolo a euskadi

y en esta iniciativa también estamos instando a ello creo que es el momento también de dar pasos en euskadi

porque es muy importante y esto quería comentarlo

es verdad que no tenemos que fragmentar la pobreza yo les he dicho cuando he explicado que para nosotras es un marco conceptual

desde luego no se puede entender sin todo el abanico multidisciplinar

y por ello además este primer punto que este estudio está pensado para que se haga con ese enfoque

a nivel desde la comunidad pero también a nivel estatal que impliquen la reducción o gratuidad en el coste de los productos de higiene menstrual y a realizar un informe sobre esa llamada tasa rosa también aquí en euskadi quería acordarme porque leyendo estos días artículos sobre el tema la verdad es que me sorprendió que kenia por ejemplo fue el primer país en anular

y hay en muchos territorios acciones muy concretas pero yo creo que el paso que estamos dando

para llevar a cabo otras muchas iniciativas que pueden ser mucho más tangibles por la ciudadanía como las que proponía la señora etxebarrieta que mencionaba algunas como lo de los dispensadores u otros muchos asuntos hace poco en el ayuntamiento

unas horas al mes de libre disposición

de cuestiones muy concretas que la ciudadanía entenderá que es aterrizarlo pero yo creo que desde el parlamento lo que nos correspondía hoy es lo que hemos hecho y por lo que yo creo que hay que felicitarnos todas porque es una cuestión colectiva y quiero deciros

sí yo creo que

que hemos intervenido hoy estamos de acuerdo en que evidentemente todo lo referente a la pobreza

se ha de debatir dentro de un debate integral también de la pobreza

integrar dentro del plan de lucha contra la pobreza evidentemente señora garrido nosotros sabemos que la competencia del iva es estatal por eso dentro de nuestra iniciativa

a apoyar cualquier iniciativa que vaya a nivel estatal dirigida al apoyo

reducido o productos de forma gratuita señora martínez

solemos cumplir los compromisos a nivel estatal no todos los compromisos que se pueden asumir dentro de un acuerdo de gobierno

grupos políticos que hemos gobernado

no todos los compromisos que se asumen en un acuerdo de gobierno se cumplen desde el punto desde el primer momento se tienen que cumplir a lo largo de toda la legislatura

de incluirlo dentro de los presupuestos generales de este año no fue así eso no quiere decir que ese compromiso no está encima de la mesa y no se vaya a cumplir posteriormente yo creo que hoy hemos llegado

menstrual sobre la tasa rosa que está encima de la mesa que es un debate que está ahí

en cuenta dentro de la agenda dos mil treinta y como debates que están encima de la mesa es bueno debatirlos y hablar aquí dentro del parlamento y creo que hemos llegado a un buen acuerdo donde se recogen una serie

de elaboraciones de estudios de diagnósticos adoptar dentro del mismo posibles medidas que se pueden incluir dentro del plan

que tenemos y eso es importante y es bueno siempre es bueno avanzar y mejorar y poder incluir cosas que puedan mejorar en general
la vida de los ciudadanos y ciudadanas y en particular de las mujeres nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

suman días a la vida pero no vida a sus días aurretik ere esana dut

una y otra vez a reflexionar de manera conjunta sobre el modelo por no entender la magnitud de lo que se regula se llega hasta aquí por las decisiones que se toman

erantzukizunez aritu nahiko nuke me quiero centrar en la atención

o trabajo que merece el cuidado de las personas que viven en residencias sus familiares y las trabajadoras de los mismos ze uste dut komeni dela gogoratzea

handi bat da gizarte moduan es un fracaso colectivo que exige una autocrítica comunitaria herri duin batek gobernu duin batek

no podemos salir de esta sin saber qué es lo que ha pasado exactamente

y cuidados profunda en profundidad de las personas mayores para que lo ocurrido no vuelva a repetirse horregatik euskal herria bildu

de los centros residenciales para personas mayores y a partir del análisis en virtud de las funciones que le atribuye la ley

a la alta inspección de los servicios sociales y tras escuchar a las administraciones los gestores

usuarios y usuarias y familiares de los mismos bueno

que puedan servir para cambiar el decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve

da forma es la columna vertebral de lo que es el modelo de atención para las personas mayores en los centros residenciales

lo que buscamos hoy es analizar lo que ha ocurrido en profundidad y establecer las condiciones y garantías para garantizar la dignidad y la calidad en la atención a las personas mayores beste behin

nosotras creemos que no se puede dar este tema por amortizado

no podemos permitir que se siga mirando hacia otro lado para ver si este tema va pasando y se olvida es una cuestión de asunción de responsabilidades

gertatutakoa ikertzeari y nosotras tenemos claro que no se puede salir de esta sin abordar un debate serio y sosegado

la mayoría de los grupos de esta cámara ha extraído una conclusión incontestable a día de hoy que el modelo residencial actual no garantiza

porque todas estamos recalcando la necesidad de reflexión en torno al modelo de residencias todas estamos de acuerdo en que los estragos de la pandemia los estragos que se han causado en las residencias respondían por un lado a la novedosa situación

lo suficientemente rápida eficaz y preventiva y ahora coincidimos todas en la necesidad de reflexión

desde mi grupo parlamentario desde elkarrekin podemos e izquierda unida entendemos este proceso dentro

que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de cuidados de apoyos socioeconómicos necesarios para las personas y para las comunidades

para asegurar que la atención de los cuidados viene marcada por el derecho a las personas al cuidado digno y por el derecho a las condiciones laborales dignas de los trabajos de cuidados

sin embargo no consigue transformarse en un acuerdo parlamentario

de revisión del decreto de residencias aun compartiendo todas

debilidades estructurales del sistema hasta tres veces se ha aprobado dicha revisión

hasta aquí la revisión del modelo residencial no surge a raíz de la pandemia sino que la pandemia agudiza la insostenibilidad del modelo que veníamos manteniendo quiero recordar en una de mis primeras intervenciones en este parlamento cuando planteábamos

una ponencia de cuidados fue también mi grupo en febrero cuando presentó una moción sobre medidas urgentes para garantizar la efectividad y adecuación de los protocolos covid en los servicios sociales residenciales en esa ocasión

descafeinada digo en cuanto a compromiso real pero estaba cargada de intencionalidad en cuanto a querer establecer un marco

no interesaba en ese momento dar legitimidad a un proceso de reflexión más amplio cosa que luego sí que ha interesado para anunciar un proceso de reflexión pero en el marco

no ha sido la única vez que debatimos esto ni que abordamos la necesidad del cambio de modelo este modelo y lo saben lo saben las personas usuarias lo saben las personas trabajadoras lo saben hasta las

cuando plantean la necesidad de revisión del decreto la cuestión es hasta cuándo vamos a seguir posponiendo este ejercicio necesario y a costa de qué

el segundo que no se quiere impulsar un liderazgo desde gobierno vasco que hemos repetido en un montón de ocasiones

cercanos con la generación de un consenso y un cambio profundo y sin embargo para mi grupo parlamentario estos son los tres elementos indispensables evaluación liderazgo y participación ebaluazioa

pero estos tres aspectos creemos que para el gobierno no son importantes ni buscan un consenso amplio que permita construir un modelo de país

vertientes o bueno o sí tienen un modelo de país ese que sigue apostando por no desplegar la cara pública y comunitaria del cuidado para limitarse a los apoyos al cuidado no profesional

interesante pero bueno vuelvo sobre esos tres elementos que consideramos importantes desde mi grupo parlamentario y me gustaría explicarles por qué el primero el tema de la evaluación

ambas herramientas estratégicas y políticas en la construcción de un modelo de país porque creemos que estas son las decisiones que deberían estar construyendo

materia social en políticas sociales y la protección social son elementos generadores de cohesión social y cohesión territorial además del derecho subjetivo de la ciudadanía al final

y no entendemos las reticencias del gobierno para llevar a cabo estos procesos tan necesarios

los usuarios y las usuarias de las residencias tampoco comparten las valoraciones de las administraciones que deben velar por sus derechos es que incluso entre

y si no queremos una mirada honesta sobre los fallos del modelo pues entonces para qué revisamos una revisión del modelo para qué la planteamos y si están tan convencidas de su buena gestión pues por qué no utilizan esos instrumentos para validar y asentar la confianza

porque ni los sindicatos ni las asociaciones de familiares muestran confianza sobre los servicios de inspección de las propias diputaciones porque son inspecciones sobre sí mismas esto se ha debatido en las juntas de bizkaia de gipuzkoa y de araba y toda la oposición ha estado de acuerdo y mientras tanto

autocomplacencia y balones fuera de una administración para otra y esta es la sensación de abandono que tiene la ciudadanía esto es no apostar por avances en materia de justicia social en cuanto a la participación de calidad que era otro de los aspectos

entendemos que los mecanismos de participación que están anunciando para ese proceso por prensa más que por canales oficiales

e incluso cierta desconfianza ya que solo participan

al gobierno y se están olvidando de uno de los objetivos incluidos en la propia agenda nagusi abrir los espacios de participación y la incorporación de todas las voces

creemos que en este ejercicio de participación las trabajadoras de residencias las personas usuarias y las asociaciones de familiares tienen que tener una voz nuclear porque son a quienes más afecta la planificación del modelo residencial y junto a ellas por supuesto el resto de voces implicadas

intento hacer siempre el acuerdo hemos llegado a un acuerdo con euskal herria bildu en este punto a sabiendas de que lo más probable es que sigamos sin conseguir su acuerdo

la oportunidad de la reflexión profunda estratégica sobre el modelo residencial queremos un ejercicio mayor de autocrítica del que ustedes están dispuestas a hacer y podemos seguir posponiendo eternamente el debate real sobre la necesidad de un sistema público de cuidados

y nos hará responsables también de esta falta de compromiso y valentía con la mejora de la vida de las personas

quienes insisten en que cada vez más el debate va a venir de situaciones más precarias de una población más desencantada más desafectada con la utilidad de esta cámara para alcanzar consensos importantes

trae unas consecuencias fatales para todos y para todas permiten que aparezcan los monstruos que se asiente el miedo y el miedo se traducen individualismo y vendrá la próxima pandemia y nos vamos a encontrar con una sociedad que no va a sumarse a la petición de responsabilidad comunitaria porque ha aprendido de nosotras

y que no valora lo público porque lo público a veces le dio de lado así que insistimos intenten dejar

pongámonos a la política real pongámonos a hacer política que mejore la vida de las personas que en esa apuesta

como decía hemos debatido en muchas ocasiones sobre este asunto a lo largo de esta legislatura de esta casi va a hacer un año de las

hemos mantenido la misma posición en este tema creemos que ha habido problemas en los centros residenciales en la gestión de los centros residenciales durante

la mortalidad ha sido muy alta en los centros

de fallecidos en euskadi había que tomar decisiones para

que estaban atravesando muchos centros en nuestra comunidad autónoma en este sentido por parte del gobierno vasco y las diputaciones forales hay que decir que se aprobó un protocolo conjunto

pero el departamento de salud elabora un protocolo que aúna criterios para proteger a las personas mayores ante el covid en los centros residenciales y también bueno se ha adaptado este protocolo saliendo otro el doce de mayo

diecinueve en los centros del ámbito sociosanitario nosotros sí que dijimos en su momento que creíamos que el primer protocolo de septiembre

adecuado para hacer frente en un primer momento a la situación de las

diputaciones forales y que hubo muchos momentos de confusión como digo para hacer frente a la situación específica de las personas mayores

residenciales en ese sentido hemos defendido en múltiples ocasiones la necesidad de hacer un estudio que analizara la situación de la red de las residencias de las personas mayores en euskadi con el objeto de identificar los problemas y deficiencias existentes

y poner en marcha una vez conocidas las conclusiones de dicho estudio todos los mecanismos para

otro de los clásicos que hemos traído otra de las cuestiones que reiteradamente hemos traído ya desde la pasada legislatura a este debate es la revisión del decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve

se ha hecho referencia a esta cuestión creo y aprovechando que está la señora consejera

siguiendo este debate sería conveniente que el gobierno

parece ser que puede estar en ello y que tuviéramos este decreto a la mayor brevedad posible por otra parte creemos que

de servicios sociales no se está ejerciendo adecuadamente

en todas las iniciativas que debatimos sobre estos temas también introducimos una referencia concreta a esta cuestión y finalmente nos parece importante que por parte

del gobierno vasco tanto el departamento de salud como el de políticas sociales

departamentos que actúan en el ámbito sociosanitario

los protocolos que sean necesarios para hacer frente

que se tengan que adoptar para evitar contagios y medidas de protección

presentada tengo que decir que coincidimos con algunas de las cuestiones planteadas

gonzález ha dicho o comisión de investigación o auditoría externa yo creo que no se pueden mezclar

estas cuestiones yo creo que procede en este momento hacer un análisis riguroso una auditoría externa que es lo que nosotros pedimos y posteriormente una vez

y analizadas las conclusiones de esa auditoría externa poder proceder con otros mecanismos que puedan ser necesarios pero yo creo que ahora lo que urge es tener ese análisis exhaustivo de la situación de los centros residenciales lo que ha pasado durante la pandemia

radiografía concreta de las residencias en euskadi y luego ya veríamos quiero decir primero yo creo que hay que empezar por ahí por eso en la enmienda de transacción propuesta

del personal de los centros residenciales para personas mayores en la comunidad autónoma vasca somos conscientes de los efectos que la pandemia del covid diecinueve ha tenido sobre los

residenciales y por eso desde el principio y desde el gobierno vasco se adoptaron diferentes medidas para ir paliando

se sufrieron sobre esos centros residenciales y que evidentemente muchas de esas medidas que iban dirigidas a proteger la salud de los

dentro de las mismas de los trabajadores y tuvieron también que sufrirla los familiares

de la pandemia según estuviera la situación del momento para hacerlas lo más llevaderas posibles de las mismas pero lo que sí es cierto es que no es la primera vez que eso lo debatimos aquí sino que ya es la tercera de septiembre a aquí y la última fue el veinticinco

de este año en una moción presentada por el grupo elkarrekin podemos relativa a la dotación de medidas urgentes para garantizar la efectividad y la adecuación de los protocolos del covid diecinueve

que aunque las propuestas que planteaban en esa iniciativa

desde luego con el título eran muy similares hoy debatimos en el parlamento vasco tan similares que es que son idénticas son absolutamente idénticas la propuesta de bildu que se debate hoy se presentó el cinco de febrero de dos mil veintiuno exactamente el mismo día el grupo elkarrekin podemos presentó su moción

el veinticinco de febrero pasado y ambas iniciativas eran similares

absolutamente idénticas por eso evidentemente

hoy vamos a tener la misma respuesta pero evidentemente si hemos traído aquí el veinticinco de febrero un debate absolutamente

no vamos a cambiar la postura de lo dicho el veinticinco de febrero a lo dicho hoy porque la propuesta la enmienda transaccional y todo lo que se ha presentado por los diferentes grupos las distintas enmiendas que se han presentado por los grupos

en la moción que ya se debatió el veinticinco de febrero pasado y en cierta forma es una manera de presentar ante esta cámara

que no es la de realizar una comisión de estudio que quiere mejorar que quiere debatir para presentar propuestas porque luego cuando hablan ustedes y en su propio debate se ve lo que realmente quieren pedir o quieren hacer

la petición de la creación de una ponencia para realizar exactamente lo mismo

la cambiaron el veinticinco de febrero hablaban de una comisión de estudio pero en el fondo lo que quieren dicen estudio e investigación para pedir responsabilidades pero es que es lo que se quiere realmente conseguir lo que se quiere conseguir es el sembrar dudas iniciar esa comisión

a pedir responsabilidades en el ámbito de las medidas que se han podido adoptar en los centros residenciales desde luego

el uno de octubre por el grupo elkarrekin podemos lo que

el uno de octubre ya se aprobó aquí una enmienda transaccional firmada por el grupo nacionalistas vascos mi grupo el grupo socialistas vascos

popular ciudadanos donde ya se asumían la necesidad y compromiso de llevar a cabo la modificación del decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve

residenciales de mayores compromiso además que de todas formas ya venía asumido dentro del acuerdo de gobierno que se firmó al inicio de la legislatura

vasco y en esa enmienda transaccional también se instaba al gobierno vasco y al resto de instituciones a realizar campañas dirigidas a realizar reconocimiento del valor social de los cuidados no estamos de acuerdo entonces en la necesidad de contar con esa ponencia y no estamos de acuerdo tampoco ahora

que no está presentada con el ánimo simplemente de vamos a estudiar vamos a debatir y vamos a proponer medidas

que lo que se busca con eso es la realización de una investigación general

de la situación de las residencias en este momento y ya en la intervención de la consejera

de políticas sociales igualdad y justicia el veinticinco de febrero se puso de manifiesto las diferentes medidas que se han ido adoptando

esa situación y que se ha efectuado una coordinación reconocida además en diferentes estudios que se han llevado a cabo

diputaciones se llevó a cabo actuaciones de inspección importantes coordinadas con el ámbito de salud y el ámbito de políticas sociales que fueron alabadas

y tenidas en cuenta y puestas en valor todo eso ustedes no lo han tenido en cuenta que se han ido adoptando medidas sí que la situación que se ha vivido desde que se inició la pandemia por supuesto que evidentemente se adoptaron medidas que traían o han traído dificultades tanto para los residentes como para las familias

que se adoptaron buscando la protección precisamente de esas personas mayores ante la situación de la pandemia porque eran un colectivo vulnerable y además que luego se han ido adaptando y cambiando a medida que también la situación de la pandemia ha ido cambiando a lo largo de la evolución

de la misma desde el inicio hasta ahora nosotros en la moción

presentamos una enmienda a la totalidad que se acordó y entonces lo que se pedía era precisamente que se instaba al gobierno vasco a adecuar ese decreto

de personas mayores esta iniciativa es como he dicho absolutamente idéntica a la que debatimos ese día y por tanto cuando se presentó

esta iniciativa decidimos que como ya habíamos presentado enmienda a la totalidad

y además en ese momento se había aprobado no íbamos a presentar una enmienda a la totalidad a la iniciativa presentada hoy

repetitiva de la anterior entonces no tenía ningún sentido presentar en dos iniciativas exactamente iguales

se aprobó ya en aquel momento no tenía ningún sentido la presentación de esa enmienda a la totalidad por eso nosotros lo que vamos a hacer hoy es

en contra desde luego de la enmienda transaccional que se ha firmado hoy entre el grupo eh bildu y el grupo elkarrekin podemos porque además es absurdo absolutamente la misma que se llegó y se acordó el veinticinco

pasado y supongo que evidentemente como han manifestado el resto de grupos parlamentarios de la cámara ante la misma plantearán la misma

me imagino el grupo popular votó a favor de esa enmienda transaccional en su día pues no sé lo que harán no sé lo que harán

lo que sí nosotros evidentemente vamos a ser coherentes no hemos presentado una enmienda a la totalidad porque ya lo presentamos en aquella moción que se debatió y que se aprobó y por tanto hoy votaremos en contra de esa enmienda transaccional

iragarri zuen hausnarketa prozesua irekitzea para reconocer lo sucedido una pausa necesaria para evaluar y valorar lo que había y lo que hay una reflexión pausada y sobre todo compartida para ser capaces de vislumbrar el deseado futuro que mejor se aviene a las necesidades y deseos de los vascos

es uno de los compromisos del programa de gobierno eta gure taldearen ustetan konpromiso oso garrantzitsua da

al ejercicio del derecho subjetivo de los derechos sociales uste dut argiago eta espreskiago ezin dela esan

para saber qué es lo que se plantea en esta iniciativa porque es muy claro es una comisión de investigación

y para que después de realizada una auditoría independiente sobre el tema escuchar a los familiares a los gestores a las administraciones a los familiares a los

se pudieran obtener una serie de conclusiones se pudiera tener también el informe que en función de sus funciones atribuidas por ley le corresponde

se pudieran recoger una serie de conclusiones y con todo eso con todo eso se pudieran realizar las modificaciones en el decreto que como ya he dicho es la columna vertebral

de lo que es la atención a las personas mayores en los centros residenciales es que yo creo que la iniciativa es bastante simple vamos que no es que nos haya pillado usted es que es así es lo que se plantea y desde luego traeremos esta iniciativa o las iniciativas que hagan falta con respecto a este tema las que hagan falta aunque a usted le parezcan repetitivas ze gai honek

de una comisión de investigación para saber lo ocurrido ezetz esango diozue kanpo auditoria bati

baina ez duguna permitituko da beste aldera begiratzea no buscamos culpables de lo ocurrido pero no vamos a permitir que esto se dé por amortizado

y creemos que además como sociedad no lo podemos permitir no nos lo podemos permitir y me gustaría que se pudiera reflexionar en esta cámara sobre cuántas comisiones ponencias grupos de trabajo se han creado en este parlamento sobre diferentes temas y si el cuidado de dieciocho mil personas no merece la misma atención

dela investigar lo ocurrido abordar un debate serio y sosegado

es un deber político y moral es una cuestión de responsabilidad y de decencia política gertatutakoa ikertzea ardura eta dezentzia politiko

hasteko pedir responsabilidades

es una labor que nosotras no podemos ignorar de hecho es una labor que nos toca que nos toca por responsabilidad política y yo creo que

todos sus procesos consigo mismo consigo mismo o con sus organizaciones afines los cuestionamos claro que les cuestionamos los cuestionamos aquí pero no los cuestionamos solo nosotras los cuestionan en la calle también

todos los agentes todas las asociaciones todos los sindicatos con los que no se cuentan para esos procesos participativos

queda muy bien escritos pero luego aterrorizados lo que vemos es

consigo mismas que se evalúan a sí mismas hay que poner mecanismos para controlar la política y si ustedes estuviesen en la oposición estarían haciendo exactamente lo mismo

es nuestro papel poner mecanismos para controlar la política que se hace lo que traemos aquí es un mecanismo un mecanismo de transparencia la transparencia como indicador de calidad democrática porque hay hay sospechas hay sospechas de que no se ha conocido

en las residencias ni con los fallecidos ni con las personas fallecidas y con los datos de las encuestas de satisfacción que hemos hablado otras veces que no dan los mismos datos

territorios tres modelos el papel de la alta inspección

es fundamental no cuestionamos para nada ni su existencia ni todo lo que hace pero sí cuestionamos que no tiene una buena dotación de recursos eso ya lo dijimos en los momentos en los presupuestos y ahora lo volvemos a decir

dotada de recursos tendría capacidad para llevar a cabo este tipo de evaluaciones y que se permitiese trabajar desde la cultura de la evaluación permanente

y bueno para acabar decirles que los ejercicios de autocrítica siempre son buenos y nosotras los hacemos

para nosotros era importante que otra vez en este

quedara claro la posibilidad ya de hacer una auditoría externa sobre la situación de los centros residenciales lo que ha pasado durante sobre todo los primeros momentos de la gestión de la pandemia las deficiencias que han aflorado todos los problemas que han existido yo creo que a esa realidad no se la puede obviar y no se la puede obviar y es que este gobierno no debería

poniendo en marcha aquellos instrumentos pertinentes para desde luego subsanar todas las deficiencias que se hayan podido detectar y por lo menos para el grupo

actuar haciendo muchas más cosas de las que está haciendo hasta este momento por otra parte la revisión del decreto creo que es algo ya urgente creo que ya es algo que llevamos reclamando en este parlamento con acuerdos concretos

inspección un instrumento que específicamente aparece en la ley de servicios sociales y que además es competencia

llevarlo a la práctica y por otra parte la revisión de los protocolos dicho esto sí que tengo que decir que tenemos matices en relación a la comisión de estudio que proponen los grupos eh bildu porque creemos que precisamente lo primero que tenemos que tener

externa y una vez que tengamos esa auditoría externa con sus conclusiones

esa auditoría externa y luego en su caso si fuese conveniente ya plantearnos el abrir una comisión de estudio en el parlamento vasco besterik gabe eskerrik asko

sí bueno yo creo que nadie en ningún momento ha mirado para otro lado y el gobierno vasco en ningún momento desde el principio ha mirado para otro lado han quedado claros tanto hoy como en los otros plenos en los que se ha debatido en iniciativas muy similares

medidas por parte del gobierno vasco que se han tenido que ir cambiando y adaptando a las situaciones que en cada momento se vivían en la pandemia evidentemente ahora mismo afortunadamente no estamos en la misma situación que estábamos en el momento inicial de la pandemia tenemos unas medidas adaptadas

la situación evidentemente seguimos en pandemia no podemos bajar la guardia tenemos que seguir adoptando medidas porque a pesar de que estamos mejor todavía

generar otros brotes etcétera eso es una realidad pero se están adoptando medidas

lo que quieren es realizar desde el principio y han ido cambiando el nombre vamos a pedir una ponencia y ya lo he dicho vamos a poner no le quieren llamar en la

ya lo he dicho pero no quiero eso lo que quiero es que se abra una investigación que se pidan responsabilidades etcétera la necesidad de la revisión evidentemente yo creo que lo compartimos todos si es que eso es algo que lo compartimos yo creo que todos los grupos parlamentarios cuál es

quién tiene que hacer esa revisión ustedes desde el principio están diciendo

buscan ahora comisión de estudio que es en realidad de investigación pero que se haga aquí no

es que el gobierno vasco está realizando esa revisión y está dando esa participación no está dejando

sin participación a distintos colectivos afectados por esta situación se está dando esa participación pero esa revisión le corresponde realizarla al gobierno vasco y ustedes llevan

intentando que esa revisión se efectúe desde el gobierno vasco desde el principio y eso es lo único que nos diferencia

pues estamos todos de acuerdo que en dónde está la cuestión

que sea el parlamento el que efectúe ese trabajo y nosotros hemos dicho que no desde el principio que nosotros consideramos que esa revisión le corresponde efectuarla al gobierno vasco tanto de la situación de las residencias de qué modelo queremos a futuro

en esa revisión evidentemente se van a contar y van a participar los diferentes colectivos

y ya recogimos dentro de nuestro acuerdo de gobierno el compromiso de realizar una revisión de todo el modelo de cuidados entonces eso ya estaba en nuestro acuerdo de gobierno desde el principio era

va a llevar a cabo y señora gonzález la necesidad de un sistema público de cuidados estamos todos de acuerdo no solamente es usted o su grupo los únicos que consideran

es que en esta comunidad autónoma eso lo hemos tenido muy claro no de ahora después de la pandemia

de siempre y hemos tenido un sistema de protección

público de servicios públicos que evidentemente

tenemos nuestras herramientas estamos intentando además mejorarlas en nuestros servicios públicos a través de la renta de garantía de ingresos etcétera etcétera pero nos hemos dotado y hemos contado siempre con un sistema de protección mayor al que tienen muchas otras comunidades autónomas para nosotros siempre ha sido

y lo va a seguir siendo y se va a seguir trabajando en esa línea la única diferencia en este fondo de la cuestión es quién realiza esa revisión y nosotros lo hemos dejado

yo creo que algunas veces deberíamos de que cuidar deberíamos de cuidar eh decir que el cuidado que se da en las residencias no es un cuidado digno

dónde están los cómo ha dicho el interés partidista

que con todos los agentes que he mencionado en mi primera intervención usted cree

los familiares los usuarios los sindicatos

y otros que bueno porque la lista es larga usted cree que tenemos tantos sí sí

usted cree usted cree que son afines a nosotros usted lo cree porque usted ha hecho

bueno tal vez si dejara de hacer de bastón de algún otro grupo y se acercara a hablar

decía que qué haríamos nosotros si estuviéramos en la oposición pues no lo sé

es decir bastante bastante menos de lo que predican por los demás